la sesión agradecemos al parlamentario borja semper la

de los parlamentarios y parlamentarias en la constitución de este parlamento

de la mesa ni la ley electoral ni los precedentes históricos de la constitución de este parlamento que es la onceava sesión han

y la mesa hemos necesitado votar para ver la oportunidad de su propuesta y por mayoría absoluta hemos considerado que no procede salvo el voto de la parlamentaria

por lo tanto consideramos que no procede la propuesta hecha por

su aportación han sido presentadas las siguientes candidaturas

pero no es una cuestión de agradecimiento es una cuestión de cumplimiento de la ley como quiero recordarle que

también a esta institución no es nuestra intención entrar en un debate con usted aquí hoy en todo caso viendo que la acusación es absolutamente cerrada lo que queremos es que conste formalmente

muchas gracias han sido presentadas las siguientes candidaturas

a la presidencia de la mesa del parlamento vasco por parte del

pnv ha sido presentada bakartxo tejeria

no habiendo más propuestas a la presidencia vamos a proceder a la elección mediante votación secreta ya

damborenea ha explicado exhaustivamente los artículos o sea que me ha comido el terreno

hacemos más rápidos los procedimientos administrativos porque antón damborenea ha leído todos los artículos que competen a esta mesa

bien vamos a proceder a la elección mediante votación secreta por papeletas de las candidaturas presentadas en este caso la elección de presidente

cada parlamentario o cada parlamentaria ha de escribir un solo nombre en la papeleta todo el mundo tiene papeletas

que nos apoya en el parlamento resultará elegido o elegida

la mayoría absoluta de los miembros de la cámara la votación se iniciará a partir del señor o la señora

votos a favor de la parlamentaria bakartxo tejería treinta y siete votos en blanco treinta y ocho

por favor puedes sacar la bolita berriz

hemos revuelto mucho revuelve berrogetairu tamairu

berrogeita hamairu a ver nombre

de mesa la parlamentaria bakartxo tejeria vamos a hacer

hautatuko ditugu biak batera los vicepresidentes que ha propuesto el grupo parlamentario bildu son

y el grupo parlamentario socialista ha propuesto al parlamentario

san vicente por lo tanto haremos una votación los dos a la vez con un nombre en cada papeleta

y los que tengan más votos más nombres

eva blanco y de vicepresidente segundo txarli prieto

la misma elección vamos a hacer con los secretarios la propuesta de los grupos parlamentarios

son las siguientes las candidaturas el grupo

iturrate ibarra el grupo parlamentario de elkarrekin podemos ha propuesto como secretaria a cristina macazaga

secretario al parlamentario antonio damborenea basterrechea estos son los tres candidatos o candidatas para secretaría badakizue cada papel un solo nombre y saldrán elegidos o elegidas los que más nombres correlativamente van sacando

a favor del parlamentario iñigo iturrate treinta y ocho votos a favor de la parlamentaria cristina macazaga veintiocho a favor del parlamentario antón damborenea nueve votos por lo tanto

secretario primero iñigo iturrate y secretaria segunda la compañera cristina macazaga

bigarren vicepresidente primero

vicepresidente segundo el parlamentario txarli prieto secretario primero el parlamentario

y secretaria segunda la parlamentaria cristina macazaga con ello cesan las funciones de esta mesa de edad

taldeen artean legebiltzarrean eta baita erakundeekin eta gizarte eragileekin hoy constituimos esta cámara setenta y cinco parlamentarios

otros llevamos más de una legislatura en este parlamento

y todos necesarios hemos sido elegidos democráticamente y somos los depositarios de la soberanía popular un honor que debemos afrontar con responsabilidad desde la diversidad y la pluralidad que representamos debemos ser capaces de identificar

anteponiendo siempre el bienestar de este pueblo y de las personas que lo integran de esa forma contribuiremos a restituir a la política la dignidad y el respeto

que requieren entrega esfuerzo y colaboración y como presidenta de este parlamento reitero mi compromiso para entre todas y todos hacerlos realidad